comenzamos esta intervención recordando que el próximo veintiocho de junio se conmemora el día internacional del orgullo lgtbiq

es día para reafirmar nuestro compromiso con las luchas por los derechos negados de las personas con orientación sexual o identidad de género

desde elkarrekin podemos reafirmamos nuestra voluntad firme de continuar trabajando para avanzar hacia una sociedad igualitaria

lo hacemos en el día a día de este parlamento planteando medidas concretas hoy traemos esta iniciativa relativa a la discriminación acoso y violencia

y tenemos antes que nada que reconocer el esfuerzo hecho por todos los grupos para llegar a este acuerdo aunque también tenemos que decir que en el último momento el grupo nacionalistas vascos y el pse han cuestionado que se incluya la participación del movimiento

no entienden qué tiene que ver el movimiento feminista con las luchas históricas por los derechos de las personas

perpleja me he quedado porque lo que no se puede entender es esta historia sin el movimiento pero seguimos esta iniciativa es pertinente y necesaria porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal

las personas cuya orientación sexual o identidad de género no se ajusta a la heteronormatividad han sido históricamente excluidas ninguneadas y hubo tiempos no tan lejanos que fueron incluidas en la ley de vagos y maleantes

torturadas apaleadas y discriminadas del mismo modo que nunca vamos a referirnos a la población heterosexual como colectivo proponemos hacer un esfuerzo por ir dejando a un lado el término colectivo lgtbiq

la heteronormatividad no es el universal aunque así nos lo hayan hecho creer durante años y años

y ponemos el impulso de medidas específicas acciones positivas cuando sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de derechos y ciudadanía de todas y todos

los avances son innegables sin embargo todavía hoy en dos mil diecisiete persisten actos de discriminación acoso y violencia que se expresan de maneras muy diferentes

chistes de inmigrantes e insultos hasta las agresiones y los asesinatos el abanico de violencia es muy amplio la identidad de género o la orientación efectivo sexual no pueden ser un obstáculo para vivir una vida libre de violencia y de discriminaciones de cualquier tipo

hacia un sistema social en el que no existan relaciones desiguales de poder

queremos y trabajamos para que las personas sean valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos

al desarrollo y el bienestar de la sociedad y que todas y todos podamos participar en igualdad de condiciones en la vida política económica social cultural o de cualquier otro índole disfrutando así de los derechos humanos universales desgraciadamente los delitos de odio y la lgtbiqfobia siguen instaurada en nuestra sociedad

de episodios de violencia pública y extrema por motivos de orientación sexual e identidad de género en murcia y valladolid durante sendos desfiles del orgullo

desde aquí nuestro rechazo absoluto y solidaridad con todas las personas violentadas

aquí en euskadi según el informe del ararteko en los últimos años se han producido importantes avances legales y sociales en relación a la equiparación

no obstante venimos constatando que dichos cambios no son trasladados del todo a la realidad produciéndose todavía situaciones discriminatorias en diferentes ámbitos

es un fenómeno estructural y presente como afirman desde el ararteko en diferentes ámbitos

en las redes sociales en la administración pública en las empresas privadas en definitiva atraviesa a toda la sociedad

de esta discriminación y acoso también sucede en el ámbito educativo formal y no formal

están permeados por el sistema de valores racista y patriarcal que sustenta la discriminación el acoso y la violencia

presente conductas que se consideren no heteronormativas que trasgreda los estereotipos y roles de género que se imponen a cada sexo o en una familia que no se ajuste al modelo heteropatriarcal tradicional hegemónico

al acoso y a la violencia de la sociedad en su conjunto y del sistema educativo

se manifiesta a través del maltrato entre iguales de personas adultas hacia niñas niños y adolescentes y también de las prácticas institucionales que por acción u omisión son discriminatorias o habilitadoras de conductas lgtbiqfóbicas según la unesco

homofóbico es un problema universal y que ocurre en todos los países independientemente de creencias o culturas en nuestros centros educativos el instituto vasco de evaluación e investigación educativa realiza estudios periódicos sobre el maltrato entre iguales

se afirmaba un veintitrés coma seis por ciento del alumnado de la eso había sido testigo de que algún compañera o compañero era excluido continuamente por ser considerado gay más

durante el curso dos mil trece dos mil catorce berdindu realizó el estudio titulado

según el mismo un sesenta y dos por ciento del alumnado entrevistado en bizkaia y un setenta por ciento en gipuzkoa afirmaba haber presenciado

en el último informe sobre maltrato entre iguales de dos mil dieciséis se puede ver entre otras cosas

y por rumores por su orientación sexual un once coma nueve por ciento en el mes de marzo de este año hemos tenido conocimiento de que las aulas públicas se ha realizado una prueba diagnóstica con documentación que debían completar los niños y niñas con preguntas diseñadas desde

y por lo tanto negaba la existencia de la diversidad afectivo sexual y de modelos de familias existentes en nuestra sociedad

indirecta pero no por ello menos vulneradora de derechos estamos hablando de situaciones en las que una disposición criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar concreto tomando como referencia la definición que propone la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas gays bisexuales transexuales e intersexuales registrada el pasado cuatro de mayo en el congreso de los diputados en este tiempo de avances normativos hay una brecha entre el derecho y el hecho

y la vida cotidiana con multitud de episodios en los que todavía

se niega la diversidad sexual de todas y todos desde elkarrekin podemos entendemos que el abordaje de la discriminación el acoso y la violencia

requiere de una visión global que observe la relación directa entre discriminación desigualdad y violencia que visibilice el entramado de valores y principios que sustentan y habilitan la violencia

es una herramienta también para corregir a quienes se desvían de los valores hegemónicos consideramos que necesitamos generar nuevas políticas integrales y coherentes entre sí así como fortalecer las existentes para la igualdad de trato y la no discriminación con medidas específicas para prevenir y erradicar la violencia

desarrollarse en ámbitos diversos uno de ellos el educativo

es clave para el impulso y promoción de nuevos principios y valores en la sociedad y también para la socialización de niños y niñas en espacios libres de discriminación por motivos de orientación sexual identidad de género o de los diversos arreglos familiares

el acoso y la discriminación que por acción u omisión se produce contra la población lgtbiq en el sistema educativo antes de desglosar los puntos

de la transacción queremos volver a reconocer el esfuerzo que hemos realizado de hecho

matices en cuanto al contenido de la transacción destacamos las siguientes ideas en primer lugar reconociendo el trabajo que ya se está realizando desde el servicio berdindu eskolak

contar con el plan de trabajo para el próximo año curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho antes del inicio del curso lectivo además vamos a disponer

en los centros educativos es imprescindible para diseñar políticas públicas ajustadas a la realidad

proponemos un informe monográfico que recoja el maltrato entre iguales pero también el institucional la discriminación directa o aquella que es indirecta más sutil y difícil de identificar pero igual de lesiva para los niños y niñas

y sus comisiones de seguimiento y técnica como marco y plataforma para impulsar medidas específicas

proponemos fortalecer la coordinación y articulación de políticas ya existentes para una mayor integralidad y coherencia

ante situaciones de acoso incorporando medidas específicas para prevenir y erradicar el maltrato y la discriminación lgtbiqfóbica del sistema educativo y por último los

nos comprometemos a elaborar discursos inclusivos y a autorizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio con la diversidad sexual estaremos atentas desde elkarrekin podemos reiteramos nuestra satisfacción por haber llegado a todos los grupos con todos los grupos a esa transacción que toca diferentes aspectos de este fenómeno

y propuestas más focalizadas para la prevención y erradicación de la exclusión y violencia

muchas gracias presidenta las personas lgtbiq siguen siendo objeto de discriminación

estereotipos homofóbicos transfóbicos y sexistas arraigados dentro de nuestra sociedad es por ello por lo que para poder avanzar en una sociedad

donde se respete la diversidad sexual existente es necesaria una apuesta firme y contundente en diferentes ámbitos pero fundamentalmente

la importancia de impulsar una educación en la convivencia y el respeto a la diversidad y a los derechos de todos los ciudadanos mucho más si tenemos en cuenta que siguen existiendo en la actualidad un contexto de hostigamiento y persecución de esta población en el ámbito mundial

europeo aprobó con holgada mayoría el informe

en el que la mitad de sus integrantes decía haberse sentido discriminado y un cuarto reconocía haber recibido amenazas o ataques físicos

de género y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años aún es palpable la persistencia de un perjuicio sexual

posicionamientos políticos correctos sigue persistiendo en un plano

entre nuestros y nuestras jóvenes y que evidencia la necesidad de tener que seguir insistiendo y trabajando en este tema y sentando las bases de cara a conseguir

del alumnado ha sido testigo de actitudes homófobas como burlas insultos y rumores y casi la mitad del alumnado

sufren en el ámbito escolar toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna basada en su orientación sexual identidad de género y con el debido respeto a ellas es necesario por tanto sentar las bases de un sistema educativo en el ejercicio pacífico de derechos

con el fin de hacer efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos en una sociedad cada vez más diversa igualitaria y libre los socialistas le damos una gran importancia

por eso mi grupo parlamentario los socialistas vascos llevamos ya la legislatura pasada una proposición no de ley en marzo de dos mil catorce en la que

se quería prevenir y evitar la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación

de género y gracias a aquella proposición no de ley se incluyó

y prevención de la violencia de género todo lo referencia a la atención y comportamientos y actitudes discriminatorias al colectivo

mi grupo parlamentario defendía en aquel momento en la realización de un plan

escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género que no pudo ser pero se incluyó dentro del primero plan

y prevención en la violencia de género y se llegó a una enmienda transaccional entre el grupo nacionalista vasco el grupo eh bildu los socialistas vascos y el partido popular para seguir avanzando en el ámbito formativo educativo y de salud se está finalizando la evaluación ahora de dicho plan con el fin de realizar las mejoras que se consideren pertinente

de género que articula políticas educativas y para la igualdad de trato y no discriminación por motivos de etnia raza origen orientación sexual o identidad de género dentro de los cuales también

estas políticas y ello con el fin de poder disponer de herramientas estrategias y recursos para educar en la diversidad sexual y de género prevenir el acoso escolar y educar en el respeto a la igualdad incorporando al currículo los contenidos

también hemos seguido avanzando en esta legislatura en esta materia

se aprobó una enmienda transaccional firmada por el grupo nacionalista vasco socialistas vascos

existentes donde ya se reconocía el trabajo realizado por el servicio público

así como se instaba al gobierno vasco a continuar formando y dotando de herramientas educativas al personal docente sobre diversidad sexual de género y familiar

segura entre otros puntos es por ello por lo que vamos a votar a favor de la enmienda transaccional que hemos firmado al final el grupo nacionalistas vascos los socialistas vascos

elkarrekin podemos y eh bildu donde se recoge la elaboración

eskola se recoge la elaboración de un estudio específico sobre la discriminación acoso y violencia lgtbiqfóbica en la educación primaria y secundaria una vez finalizada la evaluación del primero plan

de género tener en cuenta para los ajustes todo lo que se haya podido ver que es conveniente dentro de esa evaluación e incorporarlo al segundo plan director y luego destacar también la necesidad de trabajar en coordinación entre el departamento de empleo y políticas sociales

dentro de este segundo plan director y luego revisar la guía de actuación y dentro de la participación para revisar esa guía de actuación señor arana nosotros evidentemente que le damos importancia

los grupos feministas pero consideramos que tenía que recogerse una definición más amplia que incluye también esos grupos feministas que evidentemente

lógicamente el movimiento lgtbiq no están excluidos por tanto

de actuación están incluidos en la expresión pero se incluyen muchas más personas dentro del mismo y luego seguir trabajando en un modelo de identidad para mujeres y hombres desde una perspectiva

que es fundamental para seguir concienciando en la sociedad y educando en esos valores y por último nos hemos comprometido a elaborar inclusivos con lenguaje inclusivo y no discriminatorio hacia las personas lgtbiq yo creo que es un buen acuerdo y por tanto

a esta enmienda transaccional entre los diferentes grupos que hoy

los agentes lgtbiq y has hecho ahí un yo he dicho los movimientos

y los expertos en esa materia los hemos mantenido o sea que solo lo que veíamos en sobra era eso estamos hablando

muy importantes el gobierno vasco trabaja en diferentes materias con muchos movimientos pero no veíamos que este fuera

el punto que estamos tratando ahora creo que es un punto del que nos podemos

y muy diferentes hemos sido capaces de llegar a un acuerdo

y cuando digo que muy diferentes y con pensamientos muy distintos voy a recordar unas palabras

de este tipo y que dijo algo que para nosotros es fundamental y que guía nuestra acción en este tipo de planteamientos él dijo la homosexualidad

aquí debiéramos decir la diversidad sexual es una condición no una ideología no es una ideología

no tratar de utilizar y aprovechar los problemas de las personas para hacer ideología y partidismo yo creo que en este tema estas palabras son fundamentales

no se refieren a la condición sino las consecuencias sociales que esa condición tiene

entendiendo que lo que se trata aquí es de resolver problemas injustos derivados de condiciones personales

de ninguna manera se pueden entender como problemáticos en sí mismos nosotros hemos llegado a un consenso con el resto de los grupos sin ánimo de debatir sin ánimo de polemizar

algunos aspectos en los que no estamos de acuerdo con las justificaciones que se han dado a ver

yo creo que precisamente llegar a una neutralidad es borrar la diversidad sexual

yo estoy recordando aquellas veces cuando se dicen los impresos

que tienen que ser absolutamente neutros pues yo creo que eso es precisamente

y sobre todo es negar a muchas personas legítimos orgullos el legítimo orgullo de ser el legítimo orgullo de ser padre yo creo y sobre todo también se trata a veces

que es hacer sentir algún tipo de culpabilidad a las personas que supuestamente y estadísticamente

diversidad sexual que es probable que sea mayoritaria estadísticamente pero esa mayoría estadística

aguantarse y nosotros no vamos a aguantar es que en nombre de esa mayoría estadística se ofenda se persiga se haga sufrir a nadie en eso vamos a estar de acuerdo en eso sí

pero me parecía importante y no sin ánimo de polemizar porque lo que no hay duda es que en algunas manifestaciones de las que oímos

y por eso vuelvo a las palabras de mi antecesor en esta tribuna

la homosexualidad la diversidad sexual es una condición no es una ideología utilizarla para fines ideológicos

la lucha contra la homofobia en sí misma no hace falta pertenecer a una ideología para luchar contra

es suficiente con ser un ser humano cabal cualquier ser humano cabal piense como piense sin necesidad de ser

visualizar la vida como heteropatriarcal o heteromatriarcal porque en esta tierra nuestra hay mucho heteromatriarcado

sin hablar de cosas como heteronormatividad

se podrían asumir en parte pero que utilizadas como herramientas ideológicas tienden a hacernos retroceder

para luchar contra cualquier discriminación por razones de diversidad sexual por eso nosotros hemos llegado a un acuerdo

que se haya puesto más énfasis en el servicio berdindu

en lo que vamos a aprobar porque estamos todos de acuerdo berdindu eskola y red eraberean vienen entre paréntesis

creo que tienen un gran protagonismo y que debemos al servicio berdindu fortalecerlo

pero debemos fortalecerlo y respecto a la participación de otros agentes sociales en el tema

la red eraberean es las iniciativas de berdindu y las iniciativas no solo del gobierno vasco sino también de este parlamento

puestas en común con los agentes sociales es una red social y por tanto como canalizadora

es muy importante me da pena que no se le haya dado aquí tal importancia ya les digo viene entre paréntesis trabajar en coordinación departamento de empleo y políticas sociales

y el ararteko me parece muy bien pero hay que fortalecer lo que tenemos y lo que tenemos es esto y hay que dotarlo de medios y luego hay que pedir una rendición de cuentas y confiar en ellos porque si leemos los informes que publican

son un servicio dedicado infatigable y verdaderamente vocacional termino diciendo que

como personas cabales nos hemos unido

a esta enmienda transaccional muchas gracias eskerrik asko bengoechea

a todos y a todas en esta ocasión venimos a avalar una amplio acuerdo que pretende dar respuesta

que es algo en lo que los socialistas nos hemos venido empeñando tiempo atrás como aquí se ha mencionado cuando la señora unzalu era consejera del gobierno vasco ponemos en valor el acuerdo y ponemos en valor el esfuerzo que ha habido por evitar posiciones finalistas

y todas las cautelas legales ante las actuaciones que se van a emprender y en las que el departamento de medio ambiente ya está trabajando porque lo que hoy avalamos es que hagamos una tarea

y damos el plazo de un mes que reconocemos que no es un plazo habitual cuando se llegan a acuerdos en este parlamento pero es un plazo perfectamente asumible

porque esta cuestión estaba en la primera línea de sus compromisos cuando los socialistas firmamos el acuerdo de gobierno con el partido nacionalista vasco y por tanto la tarea está avanzada

de que mientras tanto se aprueba este plan rector no se emprendan actuaciones en la reserva que después podrían ser revertidas hay males y lo sabemos por la experiencia en otros lugares que una vez que se interviene el mal medioambiental está hecho y que cualquier corrección posterior no dejan de ser medidas paliativas que no permiten volver al punto anterior o en su caso tras años de infinidad de trámites judiciales

y añadimos no podemos judicializar la protección del medio ambiente el equilibrio medioambiental debe ser una política transversal que debemos resolver en los foros institucionales que son netamente políticos por eso nos parece que esta resolución es especialmente prudente sabiendo como sabemos que están pendientes de resolver tres

porque alguna de las partes no se vea satisfecha con la resolución judicial no queremos un embrollo que deje en el limbo de la inseguridad jurídica las decisiones que pudieran adoptarse entre tanto en urdaibai vamos a abrir el debate real que necesita esta reserva y los socialistas vascos

facilitando la participación de los agentes de la comarca y de la comunidad científica en el proceso incorporando los mejores criterios medioambientales sociales económicos y culturales

entre otros nos parece que abrimos una gran oportunidad para que este plan rector sea no solo una declaración de intenciones en materia de protección y no

sino que pueda servir también como herramienta de innovación y progreso económico sostenible de una comarca la iniciativa conjunta que hoy nos presentan eh bildu y elkarrekin podemos se refiere a un tema importante y en su momento polémico el objetivo plasmado en el texto adicional era la suspensión de la modificación del prug de el pasado veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis como ya se ha dicho aquí el gobierno vasco aprueba la revisión de este

y en el que estaban implicados diferentes agentes hay que reconocer el rechazo

están en los tribunales el prug es el documento normativo que ordena las actividades a realizar en el suelo no urbanizable

desde un enfoque de sostenibilidad adicionalmente promueve la conservación de la naturaleza y su restauración

y la priorización de las necesidades de restauración de los ecosistemas la justificación que nos planteaba elkarrekin podemos y eh bildu hacía referencia a dos

la ley cuarenta y cinco barra mil novecientos ochenta y nueve y el decreto doscientos cuarenta y dos barra mil novecientos noventa y tres normativa que hay que tener en cuenta y no debiéramos olvidar

ad hoc que tenía como finalidad establecer un régimen jurídico especial para este entorno tal y como recoge su artículo punto uno

el acuerdo al que hoy hemos llegado un acuerdo amplio que es verdad que en estos temas no estamos demasiado acostumbrados en opinión del grupo parlamentario socialista significa por un lado el deseo de protección de la reserva de la biosfera de urdaibai

la enmienda transaccional y entendemos que por parte del partido popular seguro que también significa el deseo de tomar decisiones acertadas teniendo en cuenta el proceso judicial en el que está inmerso este tema con las tres contenciosas que hemos dicho y por tanto creemos que el texto aprobado es el más garantista para el gobierno vasco

hay que saber ceder y creo que en esta ocasión hemos sabido hacerlo por tanto creo que debemos alegrarnos porque el tema era muy polémico y desde luego creo que entendíamos

que el acuerdo inicial no resultaba difícil por tanto creo que debiéramos felicitarnos todos porque creo que hoy la reserva de la biosfera de urdaibai está más protegida que ayer

sailburu jauna lehendakari jauna egun on bueno en primer lugar quisiera fijar un poco el marco

con alguna intervención anterior se ha desdibujado un poco han acudido un poco a la caricatura la biosfera la figura de la biosfera fue

diversidad biológica la conservación de los valores culturales vinculados y el desarrollo económico sostenible

armonizar conservacionismo con desarrollo humano

siendo todo esto verdad también es cierto que los días previos a la celebración de debate y tal y como hemos podido escuchar en las intervenciones preferentes una parte importante de la cámara ha mostrado discrepancias respecto al plan alineándose

en estos momentos procesos judiciales por cierto impulsados por asociaciones con visiones muy antagónicas por estadistas que quieren menos protección y conservacionistas suele ser un buen indicativo

digamos reciba opiniones contrarias desde los dos lados

de una modificación del plan rector aprobado el año pasado de un asunto y lo conocemos bien y el señor

hemos llegado a un acuerdo de unanimidad y yo me felicito por ello y agradezco a los tres compañeros de viaje

en la transaccional apoyada por todos los grupos de esta cámara instamos a que se ponga en marcha una nueva modificación del plan manteniendo vigente la del año pasado salvo en los artículos impugnados mientras se realice dicha actuación de la norma hemos acordado también dejar en suspenso los artículos impugnados

en el nuevo articulado de la modificación que se avecina una vez fijada mi posición sobre la transaccional quiero traer al debate y compartir aquí alguna de las conclusiones que vivimos hace yo creo que sería hace mes y medio en unas jornadas sobre la

de las directrices de ordenación territorial estuvimos varios compañeros de nuestra bancada y también estuvo recuerdo el señor otero

yo creo que unos urbanistas y arquitectos de prestigio

en el blog tres de las frases que para mí son claves y que las voy a leer las voy a trascribir palabra por palabra decían

pero las normas parametrizadas y esquematizadas son un formato del pasado hay que confiar en los actores locales para que los sucesos sobrevenidos que no fueran previstos en la norma sean resueltos de forma eficaz

sino que son un ente en constante evolución yo quiero coger el testigo de esta última frase porque entronca muy bien con la tesis que estoy manteniendo en mi intervención

manteniéndonos fieles a la esencia de la ley y también a la esencia de la filosofía que arropa

el concepto de la biosfera sepamos ajustar los planes a la evolución que está teniendo su fuente inspiradora en la figura de la

objetivos de la biosfera un banco de pruebas para políticas sostenibles exportables a todo el territorio nuestro grupo no quiere como tampoco quería eusko alkartasuna que dirigió durante dieciséis años el departamento de medio ambiente

sea un escaparate existen oportunidades en el sector agrícola

que aseguran que pueden asegurar que esa segunda parte de la función

sea una realidad en la vida cotidiana de los habitantes de la comarca el gobierno ha ofrecido y ofrece en este sentido un modelo basado en el equilibrio y la sensibilidad

vivimos por parte de algunas asociaciones que derivan en la frustración y el desapego de la ciudadanía respecto de las políticas públicas en esta evolución constante

provenientes también de europa dado que como he subrayado al comienzo la biosfera debe servir de modelo para futuras actualizaciones luego comentaré

gracias señora presidenta consejeros señor lehendakari señorías

nos habla de nos lo recordaba el portavoz de elkarrekin podemos de los valores que rodean a la reserva de la biosfera de urdaibai y los valores sociales culturales

el marco jurídico especial para la reserva proteger la integridad y potenciar la recuperación de sus ecosistemas y prevé

que fue aprobado el año mil novecientos noventa y tres que tenía una previsión de modificación de diez años que en el año dos mil tres lo que se hace son unas modificaciones puntuales pero no se entra a una modificación

que así sigue como se ha relatado trece años después con algunos intentos con trabajos pero que lo que ha dado es

dos mil dieciséis este nuevo plan que denunciado en varios puntos y aspectos que son importantes y requieren de una hablamos de ampliación de suelo urbano residencial a costa de suelo rústico protegido distancias de protección de servidumbres de aguas no respetados ni de protección de riveras servidumbre de costas o protección del litoral en definitiva una serie de alteraciones como se recoge en la propia enmienda de transacción que han firmado ustedes

un entorno natural privilegiado en el que la actividad humana debe ser compatible con la preservación de los valores que dieron lugar a la creación de la reserva esto que parece tan lógico y sencillo lograr el equilibrio la compatibilidad entre la preservación de los ecosistemas de la reserva

de los habitantes de este espacio esto como les digo que parece algo tan lógico es y ha sido un conflicto casi permanente en este entorno y las tensiones son alimentadas por unos o por otros por instituciones en unos casos por personalismos en otros

paralizó bastantes desmanes proyectados para este entorno

la dificultad para que los órganos de gestión puedan avanzar en la toma de decisiones en ocasiones demasiadas dificultades

hechos al fin y al cabo que dificultan conseguir los objetivos de la propia ley

que la ley preveía esta cámara en el año dos mil diez el grupo popular presentó una proposición no de ley pensando en eso

en reactivar los aspectos socioeconómicos de la reserva se llegó a un acuerdo mayoritario pero muy poco de aquello se ha avanzado o se ha cumplido

decir que lo que ha faltado aquí ha sido consenso ha habido más

presupuesto para avanzar en muchos aspectos que hay que desarrollar en esta zona y falta una proyección de futuro

hace poco nos recordaban una empresa que ha tenido que cerrar con doscientos puestos de trabajo porque se le ha impedido adaptarse a la nueva normativa de producción esas cosas

estos desencuentros permanentes por lo tanto señorías creemos que nos encontramos ante un reto importante que es el desarrollo socio económico

y es que en la propia enmienda de transacción ustedes lo reconocen

y que quieren que se haga que nosotros estamos de acuerdo efectivamente pero que es muy didáctica la enmienda porque a quien no ha estado en el debate le puede facilitar

encontrar aquellos aspectos que han sido discrepantes o no usados

plan general de ordenación de esta zona en definitiva señorías

un nuevo acuerdo de esta cámara y veremos qué avance conseguimos con este nuevo acuerdo

el talante de su intervención habida cuenta de las críticas que he hecho

pero bueno creo que eran críticas necesarias ya he dicho que eran críticas

he dicho en mi primera intervención que no solamente no han creído en urdaibai sino que no han entendido lo que significa urdaibai y me alegra en segundo lugar ver que usted sí entiende lo que es urdaibai ver que entiende que es proteger no solamente

del medio ambiente sino también los valores culturales y el desarrollo humano porque cuando se protege un espacio natural también estamos conservando sus valores turísticos los recursos naturales que contiene o el potencial para el desarrollo económico

y urdaibai es un ejemplo único a día de hoy de lo que

humano y natural donde la cultura la historia y la naturaleza se junten con la economía para dar lugar a algo

por eso se protegió con la figura de reserva de la biosfera porque lo que había que potenciar era un desarrollo económico equilibrado y cuando se protege un espacio natural no se protege para prohibirlo todo sino solamente aquellas actividades que son incompatibles con el mantenimiento de la calidad del espacio natural he dicho en mi primera intervención que

en los años ochenta tenía todos los ingredientes para haberse convertido en la comarca más próspera en euskadi tenía

tenía agricultura tenía ganadería tenía pesca en aquel momento

que entonces todavía era incipiente la pregunta es por qué no se hizo nada

por qué tanto el gobierno como sobre todo la diputación de bizkaia durante estos veinte años han dejado

en un nivel que no es el que le correspondería por qué no se convirtió en el banco de pruebas que se ha referido usted anteriormente se podría haber utilizado la financiación comunitaria dirigida a revitalizar espacios naturales protegidos

haber llevado allí algunas de las empresas tecnológicas limpias y sostenibles

perfectamente se podría haber hecho podríamos hablar de eso enormemente podríamos hablar de por qué inama cuando ya no cabía en mujica

en amorebieta que estaba pidiendo en boroa entonces ha habido una serie de decisiones

se podría haber acometido un proceso usted lo ha dicho de adaptación de las explotaciones agrícolas y ganaderas hacía por ejemplo la producción ecológica para incrementar no solamente el valor añadido a las producciones sino propiciar la regeneración y rejuvenecimiento del sector se está haciendo ahora cuando la generación de baserritarras

y la siguiente generación ya se ha ido a trabajar al duranguesado al txorierri o a bilbao y ya no existe esa oportunidad se podría haber impulsado todo un tejido turístico sostenible y de calidad ligado al conocimiento de la cultura la historia y las tradiciones de la comarca y sin embargo tampoco se ha hecho frente a eso lo que se han promovido son ocurrencias como las del fallido guggenheim o ese festival de rock que el mes que viene se va a celebrar

y eso no son iniciativas serias no son iniciativas que vengan a desarrollar la económica de la comarca bajo un prisma de sostenibilidad

es que cuando protegemos un espacio ya no se puede hacer nada más ya no se puede desarrollar economía ni nada más no es cierto no es cierto se podrían

claro usted dice bueno es que ha habido recursos en el contencioso administrativo en los dos sentidos con lo cual ocupamos la centralidad

y yo lo que he dicho en mi primera intervención es que tanto el tribunal superior de justicia del país vasco como el tribunal supremo de españa en su momento echaron atrás un

por los que va a echar este que son uno que se vulnera el principio de jerarquía normativa con un decreto que trata de modificar las prescripciones de una ley y dos

sin tener una base científica o técnica es incurrir en nulidad de pleno derecho yo entiendo que este acuerdo al que me alegro que se hayan sumado es necesario para impedir que dentro de un tiempo

que como el anterior va a ser declarado ilegal muchas gracias

en el bando de la solución pero bueno en la praxis y en las conversaciones previas

más bien en un conservacionismo muy ortodoxo y en fin siendo culpables del boom inmobiliario español y de la ley del suelo

no me resulta coherente chirría un poquitín al oído

yo niego la mayor es un tema estudiadísimo jurídicamente por parte del gobierno y no es cierto hay estudios jurídicos en fin mucho más profundos de los análisis que pudiéramos hacer a nivel político yo

o el señor becerra otero jauna

comentan ustedes sobre la viabilidad del juicio a lo mejor tienen mejor información que yo posiblemente no salga adelante y tengo información cercana al tema

tema de participación se ha comentado aquí seis años de participación se inició la legislatura hace dos legislaturas los últimos tres años abiertos